señora garrido desde el gobierno del pp no hay otra cosa que

al acceso de los servicios públicos educación sanidad pensiones en definitiva

primero fue eliminar de la lista de productos subvencionados los analgésicos los protectores del estómago

precisamente aquellos que más necesitan quienes tienen enfermedades crónicas después se introdujo el copago farmaceútico no olvidemos que se excluía a los inmigrantes en estado administrativo irregular después se congelaron las pensiones para todos

en el resto de españa ya subieron los impuestos por irpf a la mayoría de los habitantes

como los de los funcionarios después se aplica el copago de los medicamentos para enfermedades de tratamiento hospitalario aunque se consuman en la vivienda de cada uno por eso la pregunta es qué será lo próximo qué será el copago de los medicamentos que consumen los pacientes ingresados

será el copago por la cama hospitalaria y por otro lado

nos ha leído unas cuantas bondades a su juicio de estas medidas pero no su valoración como grupo pp vasco cuál es su valoración están ustedes a favor de esas medidas porque claro aquí ya hemos visto tanto su negativa como su abstención

cuál es su valoración de estas medidas actuales y de las que puedan venir en el futuro por cierto nos reprocha que seamos

nos está invitando a esta cámara a ser insumisos porque nos reprocha

señora garrido no entiendo su discurso quiere usted explicarme si está invitando a esta cámara a la insumisión legislativa

también nos reprocha que haya comunidades autónomas socialistas que han puesto en marcha el copago es decir cumplimiento de la ley y que no pongan medidas de compensación

que haga transferencias de más recursos a las autonomías que carecen de ellos para poder compensar

estos repagos por cierto quiero decirle que la comunidad autónoma de asturias está ya poniendo en marcha medidas de compensación que usted el otro día nos reprochaba

usted dice que se trata de sostenibilidad yo le he dado varios ejemplos

cómo se pueden poner en marcha sin ir contra los pacientes son medidas que no van contra nadie buscando la eficacia como es la orientación de los sistemas sanitarios hacia los enfermos crónicos

como también por supuesto la reflexión de cuáles son los medicamentos que realmente son eficaces

la sostenibilidad del sistema sanitario no en medidas contra los pacientes nosotros no exageramos cuando alertamos de lo que está pasando

o que es equivalente a seis barras de pan o que el euro

hablamos de otra cosa hablamos de la necesidad de impedir por todos los medios

estos recortes anunciados para paliar cualquier efecto que tengan y que esté en nuestra mano hacerlo y levantar la voz de manera decidida para decir basta ya

aquí los únicos que han hablado de copago sanitario han sido ustedes fue la señora pajín habló de copago simbólico no le dio tiempo a determinar que era eso del copago simbólico al señor solbes

al señor jáuregui cuando decía también que si se quería que siga siendo universal la sanidad hay que

el propio exconsejero bengoa lo decía en una entrevista si es que los que han hablado ustedes de copago han sido ustedes

mireseñora roncal señores socialistas si alguien ha desfinanciado medicamentos han sido ustedes en el año mil novecientos ochenta y tres los socialistas desfinanciaron setecientos cuarenta fármacos

otros ochocientos treinta y cuatro ahora han salido cuatrocientos doce por lo tanto lecciones sobre desfinanciación de medicamentos las justas porque con ustedes

muchísimos más medicamentos y no lo digo yo se lo dice la abogacía del estado si la resolución

en todas las comunidades autónomas y que se establezca un tope en los medicamentos más costosos porque si no habría ese tope como dice la abogacía del estado de retirarse la resolución

cuatro coma veinte euros sino que el usuario debería pagar por ellos un porcentaje que varía como sabe del diez al sesenta por ciento en función del precio y sabemos cuál es el cuarenta por ciento de un medicamento para el cáncer de próstata

con esta resolución lo que se garantiza es que se ponga un tope

tendríamos que ir del diez al sesenta por ciento del precio y se garantiza que haya los mismos criterios y el mismo trato a todos los españoles independientemente de la comunidad autónoma donde vivan ya sé que eso ahora

se compren los medicamentos se dispensen en la farmacia hospitalaria o en la farmacia de la calle y le he dicho el ejemplo

el ejemplo muy claro antes en mi intervención

en esta resolución que ahora aprueba el ministerio con aportación del usuario

y por la que aportaban los pacientes con cáncer incluidos es que aportaban los pacientes con cáncer los pacientes que compraban esos medicamentos

entonces no se decía nada pero es que ahora estos pacientes que adquieren estos medicamentos pacientes parados no pagan nada y ustedes entonces cuando se daban estas situaciones

o no decían nada ahí está la demagogia y la responsabilidad del partido socialista

de asturias claro en andalucía pues tienen lo que tienen es que en andalucía los laboratorios de farmacia y proveedores de tecnología sanitaria han denunciado que la junta

ustedes dónde nos van a dar lecciones si donde gobiernan y por donde han pasado han dejado lo que han dejado dieciséis mil millónes de deuda sanitaria miren la situación de andalucía

estarían en todo caso para arrimar el hombro porque estas medidas ustedes saben que además las van a aplicar como las están aplicando en las comunidades autónomas donde gobiernan pero cómo en andalucía

que son más justos que los pensionistas que antes pagaban estaban todos exentos ahora pagan en función de las rentas esos a los que ustedes les congelaron las pensiones que los parados de larga duración que antes pagaban el cuarenta por ciento

pero si ustedes todo esto lo están aplicando y lo van a aplicar porque saben en el fondo que son medidas muy buenas y que son medidas de ahorro y que permite financiar otros medicamentos como les he señalado si es que se están financiando otros medicamentos mucho más costosos

y no mientan no digan que los pacientes que están ingresados pagan por los medicamentos porque no es así los medicamentos que se dan en las farmacias hospitalarias se dispensan con receta

por lo tanto menos demagogia y menos faltar a la verdad eskerrik asko

bermatu behar duela seguramente el partido nacionalista vasco discrepará en este punto porque el gobierno

de las ayudas de emergencia social para este año no se va a ampliar porque no hay dinero y que se ciñen

de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda

seguramente también nos dirá porque lo hemos escuchado que la partida económica de las ayudas de emergencia social está sujeta a disponibilidad económica y también hemos oído que el gobierno ha hecho un esfuerzo presupuestario para mantener

de este año que es la misma que el dos mil doce la misma del año anterior porque este año dicen que cuentan con mil trescientos millónes de euros menos

hablar de esfuerzo presupuestario cuando estamos hablando de cantidades de diecisiete coma tres millónes de euros además

nos parece cinismo guk

usted al señor erkoreka que parece que no tiene ningún problema para adelantar los cien millónes de euros y destinarlos a financiar las obras del tren de alta velocidad

a la financiación de las ayudas de emergencia social cuál de los dos asuntos les parece a ustedes más importante jarrai dezagun zehazten

utilizan este dinero para pagar gastos tales como

necesidades primarias como vestido educación

de unas gafas gastos de mantenimiento de vivienda por ejemplo el pago del ibi de la comunidad o del recibo de la luz

la ayuda económica de las ayudas de emergencia social para pagar la factura de la luz porque sus hijos e hijas

y esos son casos que se ven diariamente casos a los que se enfrentan todos los días

porque ellos son la ventanilla el contacto directo con estas personas

de comunicar a estas personas que no hay dinero y sino tienen que buscar la manera de

como buenamente puedan porque tengo que decir que también en este aspecto la orden no es clara y existen diferencias asombrosas entre los criterios que aplican unos ayuntamientos u otros

seguimos concretando hay muchos perceptores que esperan el dinero de lasayudas de emergencia social para pagar los intereses y amortización de créditos de arrendamiento y fíjense desde la aplicación de la nueva ley de arrendamientos urbanos y la agilización del desahucio exprés en caso de morosidad incluso con un solo mes de deuda el inquilino tiene para pagar desde que recibe el requerimiento de abono y se inicia el procedimiento de desahucio

en muchos casos las ayudas de emergencia social están impidiendo dramas como el que acabo de relatar

redistributiva en un contexto en que los ingresos habituales para una parte muy importante de la población que trabaja habiendo contribuido no llega a fin de mes

o por el cobro de pensiones de la seguridad social laguntza txiki horrek laguntzen die familia horiei

donde instamos al gobierno ampliar la dotación presupuestaria que financia las ayudas de emergencia social para que todas las solicitudes que cumplan con los requisitos

puedan ser satisfechas y que además lo haga dando la máxima prioridad

en el proyecto de presupuestos del año dos mil catorce la partida económica

presidente andrea consejero señorías hablo en nombre del grupo socialista y también

que acuden a los servicios sociales demandando ayudas de emergencia social al amparo de una ley y de una orden yque tienen necesidad estas personas tienen necesidad y esperan una respuesta

tan solo piden si es posible que se les de estas ayudas de emergencia social

amparo de una ley voy a explicar las razones que han motivado al grupo socialistas vascos a la presentación de esta proposición no de ley

ampliar la dotación presupuestaria destinada a financiar las ayudas de emergencia social en la cuantía suficiente como para cubrir los estados

y cuyos destinatarios evidentemente cumplen con los requisitos establecidos en la orden que el actual ejecutivo aprobó el veintisiete de marzo

sin embargo modifica los límites patrimoniales de las personas beneficiarias

he de apuntar que esta no ha sido la causa principal que ha disparado la demanda de las aes y esto es un dato importante la orden incorpora además

interinstitucional para la inclusión social que tuvo lugar el dieciocho de febrero en lo que se refería a los gastos de endeudamiento previo a los gastos de mantenimiento y

saben ustedes señorías cuanto supone estos conceptos en el total de las demandas presentadas en los municipios vascos pues un cincuenta y cinco por ciento

tan solo los gastos de mantenimiento suponen un treinta y cinco coma ochenta y tres por ciento

y las necesidades primarias un trece coma treinta y tres el endeudamiento es un porcentaje más pequeño un cinco coma setenta y nueve todo esto

la orden un cincuenta y cinco por ciento del total el alquiler es cierto que se sigue llevando un treinta y tres por ciento también en esta materia sin embargo esto contrasta con el hecho de que la partida presupuestaria que se dispone este año

y que el gobierno vasco haya decidido unilateralmente no ampliarla porque según dicen no hay dinero

que todos los miembros del gobierno vasco con el lehendakari a la cabeza han repetido infinitas veces y que ustedes han escuchado que su prioridad son las personas y que las personas son el centro de las políticas y quiénes son los que piden

personas de ideologías varias pero personas he de recordar el artículo noventa y uno de la ley dieciocho barra dos mil ocho para la garantía de ingresos y la inclusión social

han oído ustedes bien el deber de consignar anualmente en los presupuestos generales de la comunidad autónoma del país vasco los recursos económicos suficientes

económicas previstas en dicha ley y en dicha ley no dice si hay dinero o no hay dinero por otro lado ante el argumento

no son un derecho subjetivo decir que la concesión de las mismas deben estar basadas en el diagnóstico social actual así como en considerarlas como preventivas y paliativas de situaciones de exclusión social

garantizando que responden a las necesidades de las personas en los momentos críticos es preciso que el gobierno vasco entienda que las modificaciones que incorpora este año la orden reguladora de las aes del veintisiete de marzo el aumento del paro que sufre nuestra comunidad autónoma y las nuevas

sí señores nuevas situaciones de pobreza y exclusión social han derivado en un incremento de solicitudes registradas en los ayuntamientos y estos no pueden hacer frente a dichas demanda si no se produce

de forma inmediata de hecho a día de hoy muchos han complementado a duras penas

ya han agotado la partida consignada para tal fin o están a punto de hacerlo en una de las respuestas parlamentarias que en nombre del grupo socialistas yo he hecho al ejecutivo

con referencia a esta cuestión he de decir cuál es la situación y voy a nombrar los ayuntamientos

estamos hablando de junio por lo tanto ahora en septiembre prácticamente habrán agotado

galdakao leioa portugalete valle de trápaga duranguesado los pueblos alaveses están incorporados en lo que sería el concepto de la diputación foral de álava

en el área de bienestar social y he visto el colapso y ese ayuntamiento concretamente ha aprobado aportar de lo que ya se había consignado y a día de hoy no sabemos si llegará esta es la situación que tenemos solo he nombrado algunos de los ayuntamientos señorías entiendan ustedes que son razones obvias las que hacen necesario apelar a la cordura a la coherencia

y a las situaciones de necesidad que se están dando en todos los municipios vascos y que están siendo

esto lo está evidenciando la llamada de sos que están haciendo todos los ayuntamientos vascos a través de eudel solicitando constantemente ayuda porque se están viendo desbordados por el incremento en el número de las personas demandantes de las aes he de decir señor consejero

compareció el día veinte para explicarnos la orden y que usted dijo que en ese momento se estaban detectando

y de la prestación de complemento de vivienda y que en base a los datos que se irían dando durante el año iríamos viendo cómo iban a evolucionando y ya se tomarían medidas a día de hoy señor aburto

y las prestaciones de complemento de vivienda se han disparado usted lo sabe por las preguntas que nos están respondiendo y yo quiero apelar a la coherencia y a la necesidad

y complemente en la cantidad necesaria las ayudas de emergencia social y lo hago en nombre de todas las personas que no preguntan quién pone ese dinero van a los ayuntamientos para pedir para qué necesitan ese dinero

suscrito con eh bildu lamentar que no se hayan sumado más grupos y vamos a esperar cuáles son sus razones

estuve hablando con el partido popular y en principio

con el texto que vuelvo a repetir hemos firmado con eh bildu su portavoz explicará cuál será su voto y también he de agradecer

me hubiera gustado que hubieran suscrito este acuerdo sin embargo yo he salido aquí a defender solamente una cosa que es la necesidad de la necesidad es decir

a ninguna bancada creo que todos somos conscientes de las cuestiones y que cada uno las debe de argumentar por lo tanto puedo dar

pero a los señores del grupo nacionalistas vascos es que toca gobernar y no pueden perder la realidad del momento y mucho menos la coherencia que la que

también tiene que valer para el dos mil trece yo entiendo que ahora ya pasamos de la obligación de la ley

en sus manos nos ponemos en la voluntad del gobierno por nuestra parte nada más y muchas gracias

que estuvimos hablando ayer y hubo mucha aproximación en el acuerdo que han suscrito entre ustedes

entre ustedes este grupo lo que también está tratando de hacer es ver el grado de implicación y hasta dónde sería capaz de llegar el compromiso del partido nacionalista vasco y del ejecutivo

sondando las posibilidades de ver esas intenciones del gobierno vasco hasta dónde se pueden plasmar en ese sentido me ceñiré también a la intervención de la señora arregi que es la que va a llevar esta cuestión y a la que le corresponde obviamente su posición y sobre todo estamos haciendo ese esfuerzo desde el partido popular

en esta cámara como en otras ocasiones ha sido posible la pasada legislatura a propósito de una iniciativa del partido nacionalista vasco sobre esta cuestión

esta parlamentaria ha reproducido en sus dos primeros párrafos en esta iniciativa que hoy presenta aquí a debate sobre la cuestión de la financiación de las ayudas de emergencia social todos ya sabemos lo que son las aes porque hemos tenido además muchos debates sobre esta cuestión y hemos hecho un repaso también

recientes a raíz de los cambios legislativos en cualquier caso son prestaciones periódicas de naturaleza económica y subvencional que se destinan a personas integradas

para prevenir evitar o paliar situaciones de emergencia social

y se destinan al objeto para el que han sido concedidas su naturaleza es subvencional y queda sujeta a la existencia

así el artículo noventa y uno de la ley para la garantía de ingresos y la inclusión social señala que se consignarán en los presupuestos generales de la comunidad autónoma del país vasco los recursos

reguladas en la presente ley pero son los ayuntamientos los que gestionan los fondos del gobierno vasco destinadas a

y están como todos tenemos conocimiento dificultades para abonar las cuantías correspondientes por haber también gastado la partida prevista

el ayuntamiento de vitoria gasteiz yo me voy a ceñir los datos también

otros datos en un repaso somero y exhaustivo por la señora sarasua

euros la situación es delicada no solo para el ayuntamiento de vitoria sino para otros ayuntamientos como el de donostia el de irún

sí hubo también un acuerdo en el ayuntamiento vasco en el que se instaba

necesarias para cubrir las demandas tanto de este año como en los presupuestos del año que viene el acuerdo es así y fue posible un acuerdo entre todos los grupos con representación en el parlamento vasco por eso yo insto también a que en este caso

pues intente hacer ese esfuerzo porque como digo también la pasada legislatura

claro ustedes estaban en la oposición pero eran los que pedían por aquel entonces

la suficiencia de las ayudas de emergencia social y ahí están las palabras de la portavoz

los dos primeros párrafos de la iniciativa presentada son los párrafos que se aprobaron por unanimidad en un debate en esta cámara

es que ahora es lo que le tenemos que decir al partido nacionalista vasco que ahora son ustedes los que están gobernando igual que decíamos al partido socialista en ese momento que no cubrían todas las demandas de las aes ahora se lo tenemos que decir a ustedes

que se están disparando las solicitudes y que no se están cubriendo se lo decíamos entonces al partido socialista

en el gobierno y también que la nueva ley que se aprobó en el dos mil ocho establecía que los presupuestos de la capv tenían que cubrir de manera suficiente todas las demandas

que era que no hubiera límite presupuestario para ello eso es lo que decía la señora mendoza y que el gobierno tenía que cumplir la ley pues como ese debate lo tuvimos lo tenemos ahora sí que es cierto que quien estaba en el gobierno está en la oposición y quien estaba en la oposición ahora está en el gobierno pero es la misma es una situación de crisis económica en la que los demandantes de ayudas de emergencia social se han incrementado y también al variarse los límites patrimoniales pues también ha aumentado el número de demandantes por lo tanto creo que también

el debate en esta ocasión y por eso este grupo presentó la iniciativa correspondiente nosotros también a la vez que pedimos

suficientes para dar cobertura a la demanda en las ayudas de emergencia social y que en los presupuestos también del año que viene no solo en este año sino que en los de el año que viene se consignen las cantidades suficientes y está claro que esos diecisiete coma tres millónes de euros pues no son suficientes pues que

esa cantidad decía que también nos parece importante que a la vez que décimos todo esto y con el fin de que las ayudas lleguen a las personas que realmente

y que no haya abusos y que en el sistema esté quien tenga que estar se refuercen los mecanismos de control y seguimiento en estas ayudas para garantizar que se destinen al fin para el que han sido concedidas y lleguen a las personas que realmente lo necesitan también tengo que decir que en este sentido

por la que se establecieron más revisiones periódicas para efectivamente verificar que no solo en el momento

las otras prestaciones como son la rgi o la prestación complementaria de vivienda

no solo en el momento de dar la prestación económica correspondiente como digo se cumplan los requisitos sino que se verifique el cumplimiento de esos requisitos

durante el tiempo en que se da esa prestación para que realmente estén en el sistema y yo creo que eso todo es absolutamente entendible y yo creo que la mayoría de los ciudadanos lo entienden así

las ayudas lleguen a los que realmente las necesitan nosotros tenemos

entre el partido socialista y eh bildu porque se recogen los dos primeros párrafos

sí que es cierto que no han recogido nada de este punto final al que estoy haciendo

conteniendo coincidencias con la iniciativa y como ha dicho la señora sarasua

sí me gustaría oír a la portavoz del partido nacionalista vasco a ver hasta dónde están dispuestos a llegar y qué compromiso

sí gracias presidenta estamos de acuerdo con todo lo que se ha dicho

las propuestas registradas por cada uno de los grupos estamos básicamente de acuerdo con el discurso con los argumentos y con lo que

al gobierno vasco estamos digo básicamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho

en uno de los puntos planteados cómo no por el grupo popular en relación a reforzar los mecanismos de control y seguimiento de estas ayudas para garantizar que se destinen

concebidas y lleguen a las personas que realmente lo necesitan estamos de acuerdo en todo digo menos en este punto que habitualmente suele incluir el grupo popular cuando hablamos de las ayudas de emergencia social y no estamos de acuerdo con esto no porque no estemos de acuerdo en que efectivamente hay que realizar un control sino porque la

la atención lo que hace es orillar lo importante lo que hace es sembrar sospechas y porque al final lo que hace es equiparar el mantenimiento de las aes que es realmente importante

fraude que puede seguir existiendo no se puede comparar una cosa con la otra por lo tanto estamos de acuerdo con lo que se plantea pero no estamos de acuerdo con sembrar sospechas entendemos que las ayudas de emergencia social se puede decir tranquilamente que llegan efectivamente a las personas que

de hoy pero en todo caso llegan a las personas que las necesitan en fin ahí está también nuestra enmienda de totalidad que es la que nosotros en principio

el grupo socialista ha decidido pactar con eh bildu esa enmienda transaccional creo efectivamente que es de justicia que el gobierno vasco cubra las demandas de las aes y que amplíe la partida la situación es delicada

para las personas de tanto insistir en lo complicada que es la situación para los ayuntamientos a veces parece que podemos olvidarnos de que efectivamente

que no tienen acceso a estas ayudas que realmente necesitan

presupuestario dijimos que con toda seguridad esa cantidad iba a ser insuficiente y propusimos aumentarla por lo que ahora debemos insistir en la misma idea

al proyecto de presupuestos como una de las razones como una de las muchas razones que nos llevaron a presentar aquella enmienda de hecho entre los puntos que nosotros entregamos al gobierno como condiciones para apoyar los presupuestos estaba este el mantenimiento y la ampliación de la partida referida a las aes efectivamente ya en aquel momento

nos dijo que no tenía en absoluto ninguna intención en nuestra opinión no puede ser que en estos momentos en los que hay miles de familias en las que ninguno de sus miembros trabaja en las que no hay prácticamente ingresos el gobierno las deje abandonadas

dice e insiste que su gobierno es el de las personas bien tiene aquí una buena ocasión para demostrarlo no sé si hay margen

para que acepte este compromiso más bien parece que no pero en todo caso nosotros seguimos insistiendo en lo que hemos reflejado en esa enmienda

ya digo que tiene aquí una buena ocasión para demostrarlo el gobierno ha llegado a acuerdos con las tres diputaciones para invertir ciento ochenta millónes de euros

procedente de la relajación del déficit pero sin embargo no se les ha ocurrido destinar nada

esta crisis dicen que efectivamente no hay dinero pero sí lo hay sí hay dinero para esto y además pueden obtener más recursos públicos por otras vías

registrada una proposición no de ley en relación a nuevas medidas a impulsar para luchar más y mejor contra el fraude fiscal que si finalmente lo acepta la mesa

pues podrá debatirse en este parlamento en las próximas semanas son nuevas medidas para luchar contra el fraude fiscal nuevas medidas novedosas medidas para luchar contra el fraude fiscal que podrían tener como consecuencia

dicen que no hay dinero pero sí lo hay insisto revisen determinadas infraestructuras algunas de las cuales han sido pactadas entre el partido nacionalista vasco

que alguna de esas infraestructuras que ustedes piensan sacar adelante tomen medidas para racionalizar el entramado

tomen medidas para reducir drásticamente el sector público societario eliminen gastos superfluos que sigue habiendo muchos eliminen gastos identitarios en definitiva dediquen los recursos públicos a lo importante a lo más importante y este es uno de los asuntos más importantes la protección

que peor lo están pasando por otro lado nosotros planteamos durante el mes de julio una proposición no de ley relativa

a la pobreza infantil e instábamos al gobierno vasco a que pusiera en marcha una serie de medidas

infantil bueno es curioso la enmienda de totalidad del grupo nacionalistas vascos decía lo siguiente

insta a todas las instituciones con competencia en la materia a que de forma conjunta continúen profundizando en las medidas necesarias para erradicar la pobreza en euskadi y sin embargo rechaza ampliar las aes que

para evitar que se incremente la pobreza en euskadi entiendo por lo tanto que profundizar en las medidas necesarias para erradicar la pobreza en euskadi

no puede ser en absoluto congelar las aes sino todo lo contrario en fin

nuestra enmienda de totalidad que sin duda alguna es la mejor enmienda que se ha presentado y por lo tanto en principio y salvo que alguien pueda convencernos de lo contrario será la que nosotros finalmente votemos pido al resto de grupos que voten de manera unánime la enmienda de totalidad que ha presentado upyd

han oído bien la propia exposición de motivos establece claramente atendiendo a las disponibilidades que es precisamente lo que recogemos en nuestra enmienda a la totalidad en la instamos a que en la medida en la que sus disponibilidades presupuestarias lo permitan amplíe durante el presente ejercicio las dotaciones destinadas a las ayudas de emergencia social

conviene señalar la diferencia establecida en la ley insisto aprobada por amplia mayoría de este parlamento entre las diferentes prestaciones económicas en la misma reguladas

en sus dos modalidades como la prestación complementaria de vivienda la pcv se contemplan

dicho también otros representantes mientras que las ayudas de emergencia social las aes tienen carácter subvencional

por lo tanto no exigibles lo entrecomillo porque son palabras utilizadas por la anterior consejera de políticas sociales

así es como decidimos diseñar y regular en este parlamento

oso adierazgarriak iruditzen bazaizkigu instaba a modificar la ley si es que queríamos cubrir el cien por cien de las aes si se pretendía que fueran un gasto ilimitado

ya se modificó la ley con los votos del partido popular y del partido socialista que entonces iban de la mano para endurecer los requisitos de acceso a las mismas pero no se tocó el carácter de derecho subjetivo de las aes

por lo tanto pequeña diferencia pero de gran calado y consecuencias muy diferentes este gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante para dar cobertura a las personas que peor lo están pasando a través del abono de la rgi y de la pcv

nos parecen injustas las manifestaciones realizadas por los portavoces de otros grupos tratando de presentar a un gobierno despreocupado por las necesidades básicas de los y las ciudadanas sobre todo porque saben que no es cierto a pesar

de euros menos para preparar el presupuesto de dos mil trece mantuvo la misma cantidad para ayudas de emergencia social

exactamente la misma cantidad que el año anterior reitero

el setenta y dos por ciento del presupuesto del proyecto de presupuesto presentado se dedicaba a políticas sociales el presupuesto más social de la historia la actual prórroga presupuestaria se está ejecutando por el gobierno vasco con la prudencia

el cumplimiento y el rigor en la gestión económico financiera es lo que está inspirando la gestión del gobierno y nuestro grupo parlamentario como grupo que sustenta al gobierno y en coherencia con su actuación se regirá también por el mismo principio de prudencia

varios ayuntamientos han acordado este año y también en años anteriores

en sus presupuestos municipales para dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas también lo hace y lo ha hecho en el pasado el ayuntamiento de barakaldo y el de bilbao que ha puesto entre ayudas especiales municipales y dotaciones para el plan de pobreza

el pasado mes de septiembre datorren urteari begira

estamos convencidos además que el pacto firmado entre eaj pnv el partido socialista y el partido popular en el que también

servirá para entre todos establecer una partida adecuada destinada a ayudas de emergencia social

berriro empezaré por el señor maneiro yo entiendo que a usted la enmienda que más le guste sea la suya yo también porque su enmienda

proposición no de ley y esa proposición no de ley lo que usted pide se recoge también en la enmienda transaccional que hemos firmado por lo tanto no vote la suya y vote la nuestra señora garrido

nos ha dicho nos ha hablado sobre un acuerdo de la legislatura pasada no tiene que irse tan lejos este asunto se está debatiendo

el ayuntamiento de gasteiz sí se está debatiendo en juntas y su compañera

era una moción perfecta y exacta y que no le sobraba ni faltaba nada con lo cual no entiendo el problema porque esos dos primeros puntos y lo que ustedes aprobaron en gasteiz se recoge

enmienda transaccional que hemos firmado claro con lo que no estamos de acuerdo es con su tercer punto con su tercer punto no estamos de acuerdo mire entre las solicitudes sabe usted muy bien

el padrón municipal para conocer la unidad convivencial la hacienda estatal se consulta para saber si tienen inmuebles en el estado español

el instituto nacional de la seguridad social a las personas extranjeras se les exige un certificado de bienes del país de origen

control de estas ayudas que se hace habitualmente desde la administración

sobre el que se hace a algunas empresas a algunas personas que cobran los sueldos en b o

laboral precaria sabes lo que ocurre con esto cuando se hacen afirmaciones como esta porque esto ya desde el momento en que se mete un punto de esta manera

ya se está partiendo y se está dando por hecho que son muchas las personas que defraudan y lo único que conseguimos con eso es victimizar y estigmatizar

a solicitar estas ayudas porque tienen vergüenza y prefieren prefieren que sus familiares que sus amigos les echen una mano

que se estigmatice de esta manera a estas personas señora

siguen diciendo que no hay dinero y nosotros no estamos de acuerdo se lo he dicho antes

por lo tanto no tiene argumentos sus argumentos son vacíos como su enmienda a la totalidad no hay argumentos no se han comprometido su enmienda a la totalidad no se compromete dice que si hay disponibilidad presupuestaria

de firmar esta enmienda transaccional ahí es donde décimos que el gobierno se comprometa

ese compromiso en ese pacto que han firmado entre los tres sí se habla ya nos dice ya nos dicen que el año que viene va a existir la misma los mismos recursos los mismos que el dos mil trece que son los mismos que el dos mil doce

si no es así y en realidad quieren comprometerse por qué no han firmado con nosotros con nosotras por qué si tienen tan claro que ese compromiso va a existir por qué hoy

han tenido oportunidad y tienen oportunidad tienen oportunidad lo único que tenemos claro ahora mismo es que el dinero no llega y esta enmienda transaccional es

y que se dé una solución a todos esos casos y a esos ayuntamientos donde están poniendo el dinero ellos que algunos casos leioa sí

que no pueden que no pueden porque no les llega el dinero pues eso es lo que tenemos que garantizar eskerrik asko eskerrik asko

y de emergencia importante quiero explicar cómo y por qué hemos suscrito un acuerdo y firmado un acuerdo con eh bildu eh bildu presentó una preposición no de ley el ocho de julio

el seis de septiembre y aquí estamos ayer me pasé intentando consensuar el acuerdo porque los socialistas no somos excluyentes no excluimos a nadie

y las que a mí me han dicho es que con eh bildu no firman nosotros no somos excluyentes y por lo tanto en un acuerdo tan importante como son las ayudas de emergencia social no podemos decir quién firma y quién no firma que suscriba el acuerdo quien quiera y el que no que lo explique señorías

y podemos verter críticas hacia cualquiera de las bancadas pero la cuestión que estamos tratando es un tema que afecta a personas

que están atravesando dificultades y que no entienden nuestros cuestionamientos y que esperan nuestra ayuda porque hay algo que tenemos que interiorizar

que los ciudadanos que se acercan a los ayuntamientos a solicitar ayudas sociales no lo hacen por gusto no lo hacen por gusto y ustedes alguna vez se pueden ver en esa situación lo hacen por necesidad señores del pnv

cualquier mañana por los servicios sociales aunque soy consciente de que ustedes lo saben y que en este momento están teniendo una situación difícil pero la situación del dos mil trece

y usted ha hecho mención al ayuntamiento de barakaldo aquí está la concejala del ayuntamiento de barakaldo que ha venido a ver en directo este debate porque tienen un gran problema en su ayuntamiento que ellos están intentando resolver

yo por favor les pido piénselo piensen lo que van a votar y piensen porque ustedes dicen que su prioridad son las personas

me quedan dos minutos y medio voy a recordar las palabras de eider mendoza palabras muy respetables y lo voy a decir

estableció que los presupuestos de la comunidad autónoma del país vasco tenían que cubrir de manera suficiente todas las demandas de ayudas de emergencia social y además estableció una novedad que

el gobierno debe destinar todo el dinero que sea necesario se refería al gobierno socialista

y la mayor novedad que no habría límites presupuestarios y eso es lo que establece la ley en su disposición final en la primera concretamente establece lo que tengo pone

a través de su departamento competente en materia de presupuestos las adecuaciones y adopciones necesarias para la financiación de las prestaciones económicas reguladas por la presente ley

la que establece que no hay límites que no puede haber límites en consecuencia que el gobierno tiene que cumplir la ley

no porque nuestro grupo este en la oposición es por la ley y consensuaremos

entre todos los grupos y terminaba diciendo que no ponía en duda que en el futuro vaya haber voluntad política y que no haya habido hasta ahora para que el gobierno

en este parlamento pues que la consejera en ese momento la señora zabaleta cumpliera con el acuerdo presupuestario

entiendo que el partido nacionalista vasco hoy parece que ha cambiado de opinión o quizás de posición yo creo que de posición porque de opinión estoy segura que ustedes no han cambiado ustedes han cambiado de posición

son las mismas personas que habla la señora sarasua con nombres y apellidos y yo creo que el partido nacionalista los debe de mirar y los debe de ver porque ustedes los miran pero no los ven en fin

lo que creo que tengo que decir es que el debate no es si se destina más o menos dinero a las ayudas de emergencia social el debate es si se destina la cantidad que se necesita acorde a la situación que tenemos actualmente con la crisis económica que nos ha traído más paro y nuevas situaciones de pobreza que hasta ahora no habíamos tenido

si algo también sabe porque también de estas cuestiones hablábamos la pasada legislatura y no en vano llegamos a un acuerdo muy importante

que se endurecieran los requisitos de acceso es decir que se controlara también todo el sistema

de protección porque no en vano como entonces decía la consejera zabaleta somos una de las comunidades autónomas que más esfuerzo

de asuntos sociales se destina a políticas de protección por lo tanto nuestra posición

y esas iniciativas también que aprobábamos en relación a reforzar los mecanismos de control y seguimiento a las ayudas sociales ahí están esos acuerdos

al gobierno para ver cómo ha quedado el tema del estudio respecto a los perceptores de ayudas sociales que puedan realizar trabajos en beneficio de la comunidad se quedó que este ejecutivo hacía un estudio y veremos en qué está

puntos concretos para el tema de mecanismos de control

el que se tengan que garantizar la suficiencia financiera no quita para que en el sistema tengan que estar los que tienen que estar y no estén los que no tengan que estar y que las ayudas

que lo necesitan porque precisamente por ese esfuerzo que estamos haciendo hay que ser escrupulosos con que se cumplan los requisitos se sigan cumpliendo y en el sistema estén los que tengan que estar yo he dicho en mi primera intervención señora sarasua que tenemos muchos puntos de coincidencia salvo este tercero

bueno nosotros lo hemos incluido porque es nuestro discurso ya digo que ustedes también la aprobaron la pasada

sociales digo que nosotros actuamos con coherencia y por lo tanto hemos visto claramente que en el acuerdo que ustedes han firmado con eh bildu se recogen nuestros puntos por lo tanto tengo que decirle que vamos a votar en consecuencia

la legislatura pasada llegar a un acuerdo en relación a que los presupuestos de la comunidad autónoma se consignaran las cantidades suficientes para hacer

parlamento vasco y que el gobierno vasco diera máxima prioridad a la tramitación de las oportunas transferencias y previsión de recursos para cubrir por parte de los ayuntamientos con

pues incluyéramos estos puntos en nuestra iniciativa estos son los puntos que hemos incluido en nuestra iniciativa porque estos puntos se acordaron por unanimidad en esta cámara

socialista fue el que rebajó el siete por ciento de la renta de garantía de ingresos también hay que recordarlo porque aquí es justo también recordar todo y todos

adoptamos unas decisiones y el partido socialista adoptó esa decisión

popular y en ese momento el partido socialista le instábamos a que ampliara las dotaciones presupuestarias ahora es el partido nacionalista vasco el que gobierna y entonces el partido socialista que estaba en la oposición que pedía esto

cuando un gobierno gobierna tiene que tener prioridades y yo creo que esta tendría que ser una prioridad y que si ustedes hacen un esfuerzo realmente podrían mover partidas porque como también se ha dicho aquí nosotros creemos que

mucho gasto duplicado y que se podría hacer mucho esfuerzo y sacar dinero para garantizar la financiación de las ayudas de emergencia social en su totalidad

que en una situación de crisis económica con merma de recursos son los que en este momento están teniendo que poner

sí gracias presidenta se han intercambiado los papeles

cuando gobernaba el partido socialista de euskadi impulsaba recortes en las ayudas de emergencia social y el partido nacionalista vasco los criticaba ahora que el partido nacionalista vasco está en el gobierno

y el partido socialista de euskadi critica esos recortes esta es la realidad de los hechos

el partido popular que critica los recortes del gobierno vasco pero justifica lo injustificable y en concreto los injustificables recortes del gobierno de españa

son capaces de defenderlos de una manera o de otra

tratan de defenderlos y los apoyan por la vía de los hechos los recortes impulsados por el gobierno vasco no sé si con más o menos ganas los critican en todo caso el argumentario del gobierno

del gobierno anterior del gobierno de españa es básicamente el mismo no hay dinero no hay dinero para esto y nosotros pensamos que sí hay dinero para esto

y que debe haber más dinero porque hay ciudadanos que lo necesitan y porque hay margen suficiente en fin basta con haberse estudiado el proyecto de presupuestos que este gobierno nos presentó para saber a ciencia cierta que hay margen de sobra para ampliar si efectivamente hay voluntad política no hay voluntad política y por lo tanto se decide impulsar este nuevo recorte en contra de los ciudadanos con menos recursos en contra de la parte más débil de la sociedad pero obviamente que sí hay margen de maniobra

los hay insisto fraude fiscal se puede hacer más y mejor en breve si la mesa nos da permiso debatiremos aquí en breve una iniciativa de para impulsar nuevas iniciativas novedosas relacionadas con la lucha contra el fraude fiscal si llega al debate esperamos que el grupo nacionalista vasco apoye

interesantes revisen determinadas obras e infraestructuras que pudieran esperar y que no son en absoluto necesarias tomen medidas para racionalizar el entramado institucional

en todo el año dos mil trece como consecuencia de un boicot político organizado por el partido nacionalista vasco

porque efectivamente no quieren impulsar los cambios necesarios para racionalizar el entramado institucional y hacer posible que ahora tuviéramos más recursos una sola vez una sola vez en todo el año dos mil trece se ha reunido esa ponencia de duplicidades

sigue sin convocarse tomen medidas para reducir drásticamente el sector público o societario eliminen gastos superfluos eliminen gastos identitarios reduzcan incluso por qué no determinadas partidas relacionadas con la euskaldunización pensamos que lo prioritario es esto atender

recursos es cuestión por lo tanto de prioridades y para nosotros este es un asunto prioritario y por eso volvemos a pedir al gobierno vasco como ya lo hicimos en el pasado durante el no debate presupuestario que amplíe la partida de las aes

que atienda a los ciudadanos con menos recursos y deje de poner excusas para no atenderlos gracias eskerrik asko maneiro jauna eta amaitzeko

ante todo dejar claro nuestro compromiso con las personas con todas las personas y con el sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social

que se ha de gestionar con prudencia y rigor el dinero público eh bilduri blanco andreari esan behar diot

que no es un problema de disponibilidad económica pero
ha dicho que los ayuntamientos no pueden hacer frente a estas cantidades ixiltasuna
algunos hacen frente será porque hay voluntad política

en el caso del gobierno es exactamente lo mismo no tiene dinero para poder ampliar la partida y le voy a decir una cosa adelantar no es gastar

que los cien millónes esos que nos sacan a colación todos los días del tren de alta velocidad ni un solo euro

paga el estado contra certificación presentada y luego nos lo descuentan del cupo

zehaztasun gabe y no me ha escuchado lo que le he dicho porque he dicho que nos comprometíamos para el dos mil catorce a ampliar

a aes no para el dos mil trece porque le he dicho que no podemos porque no hay disponibilidad respecto al partido socialista
la verdad señora sarasua isiltasuna mesedez que después de su intervención en esta tribuna entendemos porque no quisieron

se adhirió el partido popular pero le recuerdo que los pactos

dentro del principio de sostenibilidad de los servicios sociales estoy convencida de que seremos capaces de llegar a un acuerdo y conseguiremos acordar una cantidad adecuada para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía para el año dos mil catorce estoy plenamente segura de ello respecto a las palabras de la señora mendoza que usted

le diré que precisamente las que yo he leído antes eran en contestación a la señora mendoza

entonces consejera de políticas sociales del partido socialista diciendo

por lo tanto no eran exigibles y que si queríamos que fueran ilimitadas modificáramos la ley palabras de la señora zabaleta voluntad política es evidente que la tenemos

es dinero y mire señora sarasua la diferencia entre ustedes y nosotros entre el partido socialista y el partido nacionalista es que nosotros lo que no vamos a hacer es firmar algo que sabemos que no podemos cumplir porque es cierto como ha dicho la señora garrido del partido popular que se aprobó en esta cámara una

con el acuerdo de todos unánime pero pequeño detalle que nadie ha mencionado el gobierno socialista no se pagó el cien por ciento de las aes señora sarasua no se pagó

a ver por qué convocaron elecciones antes de finalizar el plazo

isiltasuna mesedez respecto al partido popular

y tampoco le tendré que recordar que ustedes entonces eran el socio preferente

del gobierno socialista y además también le quiero recordar otra cosa señora garrido que usted en el punto anterior en el del copago farmaceútico ha dicho que
isilduko zarete mesedez el gobierno de rajoy se había visto obligado

por cómo había dejado el gobierno socialista las cuentas pues aquí las cuentas usted también conocerá de primera mano cómo han quedado y

millónes menos en mantener la cantidad para las aes por lo tanto también aplíquese el cuento y por lo menos

incongruente con sus propias palabras vertidas en el punto anterior

le voy a decir que este gobierno ni impulsa ni recorta las políticas sociales

planteado la misma misma diecisiete millónes trescientos mil euros para aes la misma cantidad con

menos de euros de presupuesto y todo ello en aras de conseguir la estabilidad presupuestaria

muchas gracias presidenta buenos días señorías intervengo en este parlamento en representación del grupo socialistas vascos con el fin de debatir la proposición no de ley presentada por mi grupo parlamentario en relación con la defensa del derecho a la libre decisión de las mujeres voy a centrar el tema

dos barra dos mil diez de tres de marzo de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo que derogó el artículo cuatrocientos diecisiete bis del texto refundido del código penal

es garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo

las correspondientes obligaciones de los poderes públicos la ley sobre salud sexual y reproductiva interrupción voluntaria del embarazo contó con un gran apoyo social

a la vanguardia de toda europa en las políticas de igualdad de oportunidades y de trato

donde se combina una ley de plazos e indicadores se establece un plazo de catorce semanas en la que se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión e informada sobre la interrupción del embarazo y sin interferencia de terceros asimismo se garantiza el acceso a la prestación

del sistema nacional de salud y por lo tanto también aquí en nuestra comunidad autónoma

una nueva regulación sobre la interrupción voluntaria del embarazo que significa

mucho más restrictiva que la ley de mil novecientos ochenta y cinco en la que las mujeres no podrán decidir sino que serán los médicos quienes decidan por ellas además

se limitará la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal creando un catálogo imposible que las clasificará

gallardón ha indicado que tendrá que tener una auténtica constatación puesto que en la ley de mil novecientos ochenta y cinco

las mujeres lo usaban como pretexto para abortar el ministro desconfía de las mujeres y hará que solo los profesionales externos

nos somete a una total tutela se regulará también la objeción de conciencia y las menores de edad deberán tener el consentimiento de sus padres o tutores sino no podrán acceder en ningún caso a la interrupción voluntaria del embarazo

en la que las mujeres españolas tenían dos opciones abortar fuera de españa si tenían recursos para ello o abortar en españa en condiciones de clandestinidad

la ley actual del dos mil diez fue avalada plenamente por el consejo de estado

argumentaba que era necesario reformar la regulación para adecuarla a nuestra realidad social y además destacaba la plena constitucionalidad de su articulado

además también muchos catedráticos de derecho constitucional lo dijeron no hay ningún pronunciamiento específico en la famosa sentencia del tribunal constitucional de mil novecientos ochenta y cinco

que excluya expresamente la posibilidad de introducir otros supuestos

según el tribunal constitucional en mil novecientos ochenta y cinco dejaba claro que no estamos en un conflicto entre dos derechos fundamentales porque los únicos derechos fundamentales implicados aquí son los derechos de las mujeres lo demás

por el estado y la ley actual de plazos e indicadores lo protege suficientemente gallardón para justificar su contrarreforma está utilizando inadecuadamente

del tribunal constitucional además el pp presentó recurso de inconstitucionalidad a la actual ley recurso que todavía no se ha resuelto y ha decidido no esperar a que se resuelva

antes de esa resolución la constitución protege el derecho fundamental de las mujeres y así lo recoge la sentencia del tribunal constitucional

con su propuesta el gobierno del pp pretende poner por delante la protección

a los derechos fundamentales de las mujeres con la ley vigente el primer paso que dimos fue reconocer a las mujeres

libremente decidida lo que implica entre otras cosas que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea posteriormente respetada pero además esta ley garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual

y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos podemos prevenir

con más efectividad especialmente en personas jóvenes las infecciones de transmisión sexual los embarazos no deseados y por tanto

garantiza también la igualdad en el acceso en todas las comunidades autónomas a las prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva así como el acceso

y de interrupción voluntaria del embarazo además establece un sistema de plazos complementado con indicadores que regulan determinados supuestos médicos

libremente con la de vida información antes de decidir

es posible la interrupción si existe un riesgo grave para la vida o la salud de la mujer o existe un riesgo grave

y a partir de las veintidós semanas solo es posible practicar una interrupción voluntaria del embarazo cuando se diagnostique en el feto la existencia de anomalías incompatibles con la vida o una enfermedad

y estos dos últimos supuestos se garantiza que sean también con dictámenes médicos la propuesta del gobierno del pp sobre el aborto nos llevaría a la cola de europa a la clandestinidad a una regulación

de malta andorra y polonia los países más restrictivos y conservadores en sus normativas pero incluso países católicos como irlanda

europeos permiten la interrupción voluntaria del embarazo sin justificación hasta la semana catorce oscilando

y las veinticuatro semanas de holanda curiosamente holanda

europea donde menos abortos se practican debido a sus políticas de educación sexual

una ley de plazos de hasta veinticuatro semanas esta es la realidad social

no se puede legislar a espaldas de la realidad y la mayor realidad es que las mujeres en todas partes del mundo tienen abortos estén legalizados o no la mejor forma de reducir el número de abortos no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros a las mujeres no

y de prevenir los embarazos no deseados por eso

apostamos por la defensa a ultranza del derecho a decidir de las mujeres porque solo así se garantiza el cuidado de su salud y de su vida y porque

porque de lo que está hablando gallardón de acuerdo con la conferencia episcopal en realidad es de eliminar el derecho a decidir de las mujeres y que esa eliminación se haga a costa de poner en riesgo su salud y la vida de las mujeres

no reducen el número de abortos aumentan el número de mujeres muertas y la pérdida de salud de las mismas

y en condiciones insalubres cuando esta anunciadísima reforma salga adelante es seguro que se estarán quitando dos derechos a las mujeres

y el de la salud estamos en el sueño de la derecha más derecha que está aplicando su programa que además conocemos derechos los justos y de pago para aquellos que se la pueden pagar hablan de modernidad pero sus referentes son antiguos hablan de reformas

es modificar una ley para mejorarla no para empeorarla

pero solo tiene uno estamos ante una involución social

no estamos conformes esta contrarreforma supondría la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres del derecho a la vida

de su derecho a la salud y a la dignidad entre otros el psoe

a cualquier modificación que vuelva a situar la interrupción voluntaria del embarazo en el limbo de la inseguridad jurídica y apoyará

porque incrementa los derechos de las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo no lesiona los derechos de las que no tienen la intención de hacerlo

es que el poder que tiene para promover las iniciativas legislativas lo tiene delegado por los ciudadanos y la constitución no por los obispos

en consecuencia tanto los obispos como el gobierno tienen que tener muy claro que en españa no se modifican las leyes al dictado de ninguna moral religiosa

de la mayoría de la sociedad amparándose en su mayoría absoluta porque la misma no es un cheque en blanco para que haga retroceder a la sociedad española treinta años no nos hagan eso a las mujeres por intereses estrictamente partidistas a las exigencias ideológicas ultraconservadoras y a la conferencia episcopal en un estado aconfesional porque no es aceptable moralmente

pido a los diferentes partidos políticos de esta cámara su apoyo

la continuidad de la ley actual porque esa ley defiende los derechos fundamentales de las mujeres nada más y muchas gracias

neoliberal y ultraconservadora que pretende imponer el gobierno del partido popular está atacando directamente a los derechos de la clase trabajadora

autoritarismo y paternalismo patriarcal por no decir casposo contra los derechos fundamentales de las mujeres y sí cómo no estamos hablando del aborto o dicho de otra manera del derecho

pero que gracias a la clase política tradicional es una posibilidad que aparece o desaparece según quien gobierne

y vislumbrando escenarios de derechos a la carta según nuestro poder adquisitivo

y de nuevo con la certeza de que nuestros derechos y reivindicaciones son de segunda

que de coarten con la capacidad soberana de cada una de nosotras a decidir sobre nuestros cuerpos sobre nuestra sexualidad

no merece el mismo cuidado que la reivindicación de otros derechos esto

desde eh bildu emplazamos al gobierno vasco a declararse insumiso

a defender el derecho al aborto como un derecho universal un derecho que debe ser garantizado en el sistema público de salud vasco como única vía para garantizar la universalidad de este derecho

dentro del sistema sanitario vasco reconociendo asimismo a las mujeres jóvenes a partir de dieciséis años los mismos derechos de decisión sobre el aborto que tienen en otras intervenciones

por otro lado lo emplazamos a poner en marcha todos los mecanismos necesarios para desarrollar y promover una educación afectivo sexual que fomente un mayor control y poder de las mujeres sobre sus cuerpos y su sexualidad

estas peticiones han quedado reflejadas en la enmienda de totalidad que hemos realizado

también consideramos necesario regular la objeción de conciencia en el sector sanitario a la hora de suministrar anticonceptivos la píldora del día después o la propia práctica del aborto debido a que no quedaría garantizado este derecho quedando bajo decisión médica

el derecho al aborto no obliga a abortar a nadie es más

el índice de abortos es el más bajo así como la mortalidad de las mujeres abortantes un caso como el de holanda por ejemplo también acompañado de una educación afectivo sexual adecuada la tutela a la que nos quieren someter es un gravísimo acto de violencia

y desde todos los ámbitos ya que es una responsabilidad de todas las fuerzas políticas y sociales de euskal herria

ante quienes se postulan en contra del derecho a la elección en contraposición a los derechos del no nacido hay que decir claramente que no cabe morales ajenas en la libre elección de las mujeres ni tutelas ni periodos de reflexión ni asesoramientos solamente aquella que va a sufrir cambios en su cuerpo y sobre la cual recae la carga de gestar y dar a luz y culturalmente

las mujeres seguiremos abortando si es nuestra decisión y lo único que generará esta ley

entre aquellas mujeres que por razones económicas no puedan ir a otro país a abortar el aborto será un gran negocio en el mercado de la medicina

por tanto concientes de que el aborto tiene múltiples dimensiones control de los cuerpos sexualidad servicio sanitarios públicos análisis económico del sistema capitalista etcétera

upyd comparte la iniciativa socialista entendida como una iniciativa preventiva ante la supuesta reforma que idea el gobierno del pp lo cual no quiere decir que la actual ley no nos parezca a nosotros mejorable ni obviamente que

afirman y sostienen quienes se oponen a gallardón nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad que creo que es suficientemente clara no ha habido posibilidad de firmar ninguna enmienda de transacción con lo cual deberemos

iniciativa del grupo socialistaque entiendo será apoyada por una mayoría de grupos no es la iniciativa seguramente que más nos habría gustado apoyar pero en todo caso

ante los supuestos desmanes que pueden aproximarse nos parece apropiado y necesario votar a favor de esa

y explica qué es lo que upyd quiere hacer en relación a este asunto en el futuro efectivamente pretendíamos que este parlamento recuerde al gobierno de españa porque creo que es un asunto importante que recuerde al gobierno de españa

y lo que ello supone que no debe admitir sino que debe rechazar cualquier tipo de ingerencia por parte de cualquier moral religiosa

en la decisión del gobierno de españa de reformar la actual ley del aborto es decir que no pueden ser los dictados de la iglesia católica

dicha reforma ni puede ser que la reforma incluya la moral de nadie también proponíamos en esta enmienda de totalidad que este parlamento inste

la reforma de la ley tal como efectivamente parece busque el máximo consenso posible entre las distintas fuerzas políticas encuentre el mejor momento para hacerlo

pero en fin pensamos que es interesante que en un asunto tan delicado como este pues no se utilice en todo caso este asunto para hacer partidismo mantener posiciones sectarias y finalmente proponemos instar al gobierno de españa a que en el caso de que pretenda llevar a cabo la reforma

que evite mezclar como la actual plazos y supuestos porque sería en nuestra opinión más respetuosa con la autonomía de la mujer adulta y porque proporcionaría una mayor seguridad jurídica tanto a las mujeres como a los médicos

es mejorable aunque desde luego no compartimos en absoluto la reforma que barrunta el señor gallardón nada más lejos de la realidad la interrupción

consideramos que esa ley crea inseguridad jurídica para las mujeres y los profesionales sanitarios y por lo tanto pensamos que efectivamente esta ley puede ser mejorable

mediante una ley de plazos que deje a la mujer gestante la decisión definitiva sobre la interrupción del embarazo dentro de un plazo legal mayor que el plazo actual de catorce semanas respecto al plazo definitivo deberá ser establecido en base al consenso médico y científico sobre la viabilidad del feto y sobre la detección precoz de malformaciones

consentida y la protección del no nacido la ley que nosotros defenderíamos debería prever la posibilidad de interrumpir el embarazo fuera de plazo si posteriormente se detectan anomalías que hagan inviable el feto o circunstancias sobrevenidas que pongan en riesgo la salud de la madre puesto que estas anomalías

podrían pueden detectarse más allá incluso de la semana veintidós o incluso de la semana veinticuatro determinadas anomalías únicamente a partir de esa semana podrían detectarse por otro lado en opinión de upyd la extensión del derecho al aborto

de dieciséis años de edad no lo compartimos esto solo tendría sentido en nuestra opinión tendría sentido coherente en el marco de una mayoría de edad legal a todos los efectos a los dieciséis años y debería abordarse en ese debate debate que descartamos que pueda producirse en el futuro en caso contrario se da la injustificada paradoja de que la misma adolescente dependiente a la que se niega el derecho al voto

o de su tutor podría sin embargo decidir abortar sin ninguna consulta

no parece razonable el amparo y tutela de las menores no es una cuestión o una coacción autoritaria sino un derecho de la menor entendemos nosotros y en caso de conflicto o mal uso de la tutela de los padres o tutores queda

a interrumpir su embarazo en fin sobre este asunto

en todo caso creo que esto es lo fundamental en el día de hoy ahí están las ideas que upyd defiende en relación a este asunto finalmente nos parece fundamental

temprana y eficaz dentro de la educación obligatoria

nosotros estaríamos dispuestos a votar a favor de la iniciativa socialista entendida como una iniciativa preventiva ante

que el gobierno actual del pp pueda promover en el futuro insisto la actual ley es mejorable la actual ley en nuestra opinión es mejorable pero en absoluto compartimos sino todo lo contrario las distintas propuestas que el señor gallardón aquí o allá en distintas entrevistas o incluso

ha venido a plantear de ahí que más allá de que tengamos una enmienda de totalidad nosotros votaríamos a favor de la iniciativa original de los socialistas

a todos señor maneiro usted ha dado en una de las claves de la iniciativa porque nos encontramos hoy aquí debatiendo sobre una propuesta que es una vez más muestra de esa política preventiva

y proclive a los eufemismos tan propia de los socialistas preventiva porque como usted decía estamos debatiendo sobre un proyecto que todavía no existe

pero como he dicho alguna vez en esta cámara su obsesión y parece que también ahora la de upyd la obsesión de los socialistas por hacer oposición les lleva a oponerse

a todo a los anuncios a las noticias que salen en los periódicos incluso es una iniciativa de instrumentalización ideológica porque mezcla interesadamente aborto y usted también lo ha dicho con la aconfesionalidad del estado y el eufemismo radica

que últimamente se usa en muchos aspectos que es el derecho a decidir en este caso sobre la maternidad la salud o la autonomía reproductiva

que se utiliza para todo pero de lo que estamos hablando y es de lo que el partido popular va hablar es si de aborto sí aborto no

en cualquier circunstancia no se preocupe en este grupo

de estar aquí planteando peros a una iniciativa que ni siquiera ha tenido entrada en el congreso de los diputados y vamos a entrar en el fondo de la proposición pero vamos a entrar desde la realidad dejando al margen las caricaturas que de esa realidad

reitera en la iniciativa el gobierno del partido popular es cierto que ha anunciado que va a modificar la ley del dos mil diez pero no lo hace por un mandato de la conferencia episcopal

casi once millónes de españoles que votaron el programa del partido popular en cuya página ciento ocho venía claramente que se iba a reformar la ley del aborto mandato que además compartimos fundamentándonos en dos criterios ninguno relacionado

la doctrina del tribunal constitucional reiterada en tres ocasiones hasta en tres ocasiones la defensa de los derechos tanto de la mujer como del concebido cuando el gobierno del señor zapatero sin haberlo incluido en su programa electoral sin formar parte de los compromisos adquiridos

segunda legislatura emprende de la reforma legislativa del aborto

en una supuesta demanda social demanda que no era tal y que esa demanda no existía fue reconocida incluso por el propio gobierno en una encuesta del cis de diciembre de dos mil ocho el aborto ocupaba el número veintisiete de los treinta y dos problemas citados por los ciudadanos y en ese mismo

se mostraban conforme con la regulación del aborto en aquel momento cifra constante cualquiera que fuera la horquilla de edad o su recuerdo de votos y estas cifras eran similares entre los votantes del partido socialista e izquierda unida pero es que es más señora sánchez en una encuesta realizada por demoscopia en el año dos mil doce

treinta y uno por ciento de los votantes de su partido del partido socialista

que tienen ustedes en el partido pero ustedes por lo visto la legitimidad se les presupone

de no contar con un informe del consejo general del poder judicial y de no ser refrendado por el consejo de estado no porque pusieron

no fueron atendidos se reformó la ley y se reformó contraviniendo la doctrina del tribunal constitucional y ahora

negar legitimidad al gobierno del partido popular para reformarla como cuando le digo once millónes de españoles votaron un programa electoral en el que nosotros sí claramente llevábamos la reforma de esta ley qué sucede señora sánchez

para decir qué es una reforma y qué es una contrarreforma creen ustedes que son portadores de una superioridad intelectual y moral superior al resto

con la ley del dos mil diez los abortos lejos de disminuir han aumentado señora

y además hay que tener en cuenta que en los abortos de este año el treinta y seis por ciento uno de cada tres

cifra que alcanza el cuarenta y uno por ciento en menores de veinticinco años y que el aborto es algo malo por todos en los debates que se hicieron de la reforma de la ley todos los que estaban a favor y los que no estaban a favor reconocían que el aborto no era malo no se puede presentar el aborto como una solución cuando lo que constituye es un fracaso político y social señorías un fracaso de las políticas de prevención de embarazos no deseados de las políticas de igualdad

como un método anticonceptivo como un método de planificación familiar sí hay reconocimientos en documentos internacionales y también se presenta el aborto como un derecho sí quisiera preguntarle señor maneiro si usted también lo considera así

en ninguna legislación y normativa internacional en ningún texto internacional se reconoce ese derecho al aborto lo que sí recogen los instrumentos internacionales

y hay que poner de manifiesto que dados los efectos negativos físicos y psíquicos para la mujer el aborto es difícilmente concebible como un derecho existe un síndrome

desde instancias médicas un síndrome que puede durar de cinco a seis años y que puede prolongarse toda la vida si no se realiza terapia adecuada por ello el consentimiento

informado un consentimiento real y efectivo y he hablado de los derechos de las mujeres que deben de contar con una información necesaria que deben

si quieren abortar o no pero también voy a hablar de esos derechos que a ustedes se les olvida porque parecen concebir al no nacido como si fuera una parte del cuerpo de la madre y usted ha dicho aquí y lo dice en su iniciativa

mire señora sánchez una está acostumbrada a las visiones distorsionadas de la realidad de los socialistas pero decir que la actual ley protege al no nacido va más allá de una visión distorsionada es simplemente una falsedad

contraviniendo lo proclamado lo dispuesto en el artículo quince de nuestra carta magna refrendado por el tribunal constitucional como le he dicho antes

de tutela en nuestro ordenamiento jurídico puso de manifiesto el tribunal constitucional que el estado tiene el deber de proteger la vida del feto que tiene la obligación con carácter general de abstenerse a interrumpir el proceso de gestación y estoy leyendo

taxativamente el tribunal constitucional por ello una ley de plazos implica una situación de desprotecciónabsoluta que es incompatible con la constitución y se lo he señalado antes así lo han puesto de manifiesto lo que pasa es que por lo visto también hay lecturas diferentes

el tribunal constitucional cuando señala que la vida humana concebida es un tertium

que es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo quince

y que esa protección incluye como garantía última las normas penales es cierto que la vida del nasciturus no puede prevalecer incondicionalmente frente a los derechos de la mujer pero tampoco estos pueden tener una primacía

ya que de ser así supondría la desaparición de un bien que no solo está constitucionalmente protegido sino que encarna un valor central

existen por lo tanto valores en conflicto que deben de ser ponderados

se deben de precisar las condiciones y requisitos para dar prevalencia a uno sobre otro y en la actual ley durante las primeras catorce semanas no existe ponderación de valores en conflicto señora sánchez no

en esas primeras catorce semanas existe vida humana y no lo digo yo se recoge así en el manifiesto de madrid firmado por más de dos mil científicos profesores y catedráticos que declaran que la vida comienza en el momento de la fecundación

con carga genética propia la ley supone también una desprotección de los menores entre dieciséis y dieciocho años una desprotección porque como les digo

que una menor de dieciocho años aunque tenga más de dieciséis tenga que prescindir del consentimiento parental implica que va a afrontar

ese aborto una ley esta que ha sido la actual cuestionada por el comité de seguimiento de las naciones unidas de la convención de derechos de las personas con

en el año dos mil ocho que da un plazo al gobierno de españa hasta el dos mil quince para modificar la ley por ser contraria a dicho convenio y que es contraria a los derechos del niño de la organización de las naciones unidas que declara

antes y después de su nacimiento y todas estas cuestiones claro que se abordarán se abordarán cuando el texto legal

al congreso de los diputados porque aunque ustedes quieran negar la legitimidad al gobierno del partido popular legitimidad que le repito está avalada por once millónes el gobierno está plenamente legitimado para proponer una reforma de la ley reforma que estará en consonancia con el compromiso adquirido
eso sí se lo digo desde ahora de preservar el derecho a la vida nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

aurretiaz aurrikusten ez zirenak eta guretzako funtsezko gaiak bi hauek entendemos fundamentales las bases establecidas por la ley vigente

y la educación en valores el reconocimiento de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios la obligación de que los padres o tutores de las chicas de dieciséis o diecisiete años sean informadas informados la mejora de la información proporcionada a aquellas personas mujeres que piensen en una interrupción del embarazo o la defensa del ámbito competencial autonómico aún sabiendo que sus votos no eran necesarios para que la ley saliera adelante en el congreso de los diputados el partido nacionalista vasco

decidió implicarse en este texto no podía cerrar los ojos ante un problema como el aborto y dejar que se aprobara una ley que no recogiera alguno de los aspectos que ya

el voto favorable a la hora de aprobar la ley vigente no es sinónimo de apoyar el aborto como solución es un aspecto tan controvertido como este

en el que las delimitaciones son tan difusas lo mínimo que podemos hacer es no imponer un código ético y moral a quien no comparte ese código y legislar para todos quizá es necesario repetir una y otra vez que esta ley no obliga a abortar tal y como ha comentado la señora urrea nuestro grupo el partido al cual represento siempre preferirá un no aborto

otras formaciones y otras personas puede que opinen de otra manera y lo respetamos por ello necesitamos una ley que ante la dramática tesitura de proseguir o no

sin apoyo de ninguna clase y que podría acabar con el futuro de una mujer contemple dentro de las condiciones que marca la ley la posibilidad de interrumpirlo o de seguir con él

también de tradición cristiana no se haya aplicado es por ello que se opta por una ley de plazos en concreto las catorce semanas que ya han comentado anteriormente sistema que es el más extendido en europa con diferencia sinceramente no creo que

como ocurre en estos países la ley contempla un plazo para que la mujer pueda reflexionar sobre su decisión final

sobre ayudas públicas disponibles para la cobertura sanitaria y para el cuidado y atención de los hijos derechos laborales vinculados a la maternidad beneficios fiscales etcétera

lo lógico es oponerse antes de que se lleve a cabo la tropelía que de reforma de ley que están previendo el partido popular que van a presentar no nos vamos a quedar de brazos cruzados y protestar

antes para intentar impedir que se lleve a cabo repito esa tropelía contra las mujeres

llegará el momento desde luego que dentro del congreso de los diputados se entrará en el debate espero que ahí entren ustedes

de todo lo que pasa sino que expliquen verdaderamente todas las razones que les están llevando a esa involución social que ustedes van a plantear dentro de la reforma de la ley del aborto que presentarán señora urrea la ley dos barra dos mil diez podía haber ido mucho más allá y señor maneiro yo estoy de acuerdo con ello pero ya me gustaría que pudiéramos mantener

en vigor y esa es la razón de la proposición no de ley por supuesto que podíamos haber ido más allá pero por lo menos

al menos que respeten lo que está marcado en la actual ley dos barra dos mil doce ya tendremos tiempo cuando evolucione más dentro de esta sociedad para poder sacar a lo mejor una ley de plazos aún mucho más avanzada señora

recordando si el consejo de estado dijo o no dijo se tuvieron en cuenta bastantes de las cosas y el consejo de estado dijo lo que he dicho yo antes respecto

ustedes vienen aquí echando la culpa a los demás de que no hacen caso a lo que dice el consejo de estado

que están poniendo encima de la mesa empezando por

educación de la ley wert y pasando por otras leyes entonces vengan aquí a decir que los demás hacen lo que ustedes ahora sí que estamos viendo que están haciendo una ley detrás de otra que los abortos han aumentado

que regula una ley de plazos empiezan a computarse los abortos dentro de nuestro país de una forma más clara porque ya

la gran mayoría de los países europeos establecen una ley de plazos

una ley de plazos que van mucho más allá que la nuestra o algunos tienen menos o algunos tienen diez otros van hasta veinticuatro

antes que más plazos pone encima es el que tiene

porque tienen una educación sexual muy buena

reducir el número de abortos no realizando la reforma que ustedes pretenden realizar por eso mi grupo parlamentario quiere que no cambien esa ley de interrupción voluntaria del

la ley del año dos mil doce no es políticamente correcto que lo haga también

al recurso que ustedes mismos han presentado y por qué tanta urgencia no existe un clamor en la sociedad

al paro y a la recesión económica pero desde luego no para cambiar la ley del aborto en lo que es verdaderamente un clamor dentro del nuestra sociedad el gobierno va a crear un problema donde no lo hay

para el conjunto de la sociedad española y visto que aunque sea un compromiso electoral del pp cambiar esta ley no lo recogía en ningún caso con la extensión que la está recogiendo la reforma que está planteando por eso el psoe se ha comprometido combatir en su caso y derogar cualquier normativa que vaya

respecto de los derechos de las mujeres ustedes están utilizando la mayoría absoluta para legislar en contra de los derechos de las mujeres y en contra de lo que quiere la mayoría de la sociedad española de una sociedad del siglo veintiuno por eso le pido

la recurran y que hagan historia en la defensa de los derechos de las mujeres y que sigan manteniendo sin cambiar una política dentro de nuestra comunidad autónoma que recoja una educación sexual un derecho a la educación sexual adecuada porque es lo único que realmente reduce

el apoyo del pnv de bildu y de upyd que han manifestado en sus anteriores intervenciones a la proposición no de ley presentada por mi

al congreso de los diputados en un asunto de gran trascendencia social nunca creí que tendría que volver a luchar en pleno siglo veintiuno

adquiridos con tanto esfuerzo pero si algo nos ha enseñado el gobierno del pp es que no hay nada seguro en nuestra legislación hoy tienes ese derecho y mañana

el programa por el que votaron once millónes de personas un programa que en el reino de españa sus ministros están pidiendo perdón por no haberlo podido cumplir pero qué nos viene a decir esos son sus argumentos díganlo de una vez están protegidos por el iglesia católica más que protegidos están obligados por los dogmas del catolicismo acérrimo el partido popular

en un momento en el que el gobierno del reino de españa está llevando a cabo los mayores recortes sociales de la historia y para el que los ataques a las condiciones de vida se han convertido en algo cotidiano

debería ser su único objetivo aquellos que defienden supuestamente la vida del feto son los que están en la mayoría de los casos de acuerdo

medidas que llevan a una sociedad más justa más injusta y explotadora

esta penalización del aborto está directamente relacionada con el reforzamiento de la familia heterosexual nuclear como principal unidad de producción económica del sistema capitalista un nuevo y reforzado orden patriarcal que facilite las medidas de recortes que vuelven a llegar al hogar y en ellos a las mujeres

y su cuidado de esta manera se sigue perpetuando y ahondando en el sistema de opresión en el que las mujeres seguimos estando a expensas del sistema patriarcal controlando restringiendo y criminalizando la interrupción voluntaria del embarazo

están en contra de que las mujeres solteras o lesbianas tengan derecho a la reproducción asistida

tirar por tierra todo el trabajo todos los años de lucha del movimiento feminista quiero recordar en esta cámara el caso de las once mujeres de basauri un hecho de gran trascendencia para la lucha feminista de euskal herria

el movimiento feminista de euskal herria con la colaboración del movimiento feminista del estado español

en su defensa bajo el lema yo también he abortado tomando las calles de bilbao para exigir su absolución ocuparon edificios escribieron manifiestos y se movilizaron y trabajaron sin descanso en un litigio clave para el feminismo la lucha del movimiento feminista sirvió para que las acusadas en su mayoría saliesen absueltas y sobre todo aprendiesen que su caso no correspondía a una cuestión personal

de todas las mujeres por ello es fundamental fortalecer alianzas con diferentes luchas y movimientos de contestación articulando el aborto de forma que podamos entender otras luchas por ejemplo la lucha transexual que comparte argumentos idénticos en torno al cuerpo

ese enemigo es el patriarcado no sabemos a quién quiere convencer el partido popular cuando dice que esto favorece a la maternidad manipula cuando anteponen los supuestos derechos los de las mujeres las personas con discapacidad y los no nacidos diciéndonos que una ley como la del aborto

queriendo vendernos que ellos son los que verdaderamente saben lo que nosotras necesitamos

porque la razón por la cual gallardón modifica la normativa no tiene nada que ver con garantizar nuestras libertades tal y como dice

los verdaderos motivos tienen que ver con unos valores religiosos que la jerarquía de la iglesia católica y el partido popular nos quieren imponer porque la iglesia y sus defensores siguen sin entender que la religión es una cuestión privada

y por más que les pese para sus ciudadanas lo décimos claramente las mujeres decidimos

gracias presidenta señora llanos quiero decirle que respeto sus ideas y que además tiene legitimidad

como lo ha hecho creo que es importante decirlo nosotros ya digo que compartimos la iniciativa socialista entendida como una iniciativa

ante determinados planteamientos realizado por el gobierno de españa en este sentido

la ley actual es perfectamente mejorable creo que es interesante que esta cámara se pronuncie digamos que

que viene planteando el señor gallardón en diferentes entrevistas en el propio congreso de los diputados ya lo he dicho antes esto no quiere decir

en absoluto quiere decir que compartamos todo aquello que habitualmente exponen de ese modo además en el que suelen exponerlo

están en contra de las propuestas del señor gallardón en todo caso insisto respeto sus ideas y creo que tiene legitimidad para defenderlas me preguntaba

rechazamos la presunción de que exista un derecho al aborto en el sentido de un derecho básico positivo derivado del derecho a disponer del propio cuerpo como si el cuerpo fuera la propiedad de una entidad ajena a él mismo que pudiera tomar decisiones

la interrupción del embarazo no debe considerarse un capricho o una anticonceptiva más y menos el ejercicio político de un derecho es sin duda un conflicto ético personal que la ley no puede aspirar a solucionar pero sí a despenalizar es decir a resolver de modo que ninguna mujer sea penaliza por interrumpir legalmente

en condiciones sanitarias creo que así completo cuál es el ideario de upyd en relación a este asunto por lo demás ahí está nuestra propuesta que está plasmada

defendemos la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo mediante una ley de plazos que deje a la mujer gestante la decisión definitiva sobre la interrupción del embarazo

de catorce semanas y respecto al plazo definitivo deberá ser establecido en base al consenso médico y científico sobre

precoz de malformaciones y con el objetivo efectivamente también sea dicho

consentida y la protección del no nacido efectivamente bien jurídico protegido tal y como reconoce la constitución y la jurisprudencia esta es

que mejore la actual ley también pensamos que el sistema nacional de salud debe garantizar la atención del derecho a la reproducción de aquellas personas que lo soliciten

incluyendo a las parejas lesbianas y mujeres solteras la orientación sexual o estado civil no debe ser causa de desigualdad de trato ni de discriminación

asistida dichos derechos están ciertamente garantizados por la ley sobre técnicas de reproducción asistida humana de dos mil seis pero sin embargo la experiencia

en la sanidad pública de algunas comunidades autónomas que han negado el tratamiento

y no discriminación es inaceptable la pretensión de reservar los tratamientos de reproducción asistida a parejas integradas por un hombre y una mujer en relación al derecho o la extensión del derecho al aborto a las menores de edad

he explicado perfectamente cuál es también nuestra posición en conclusión pensamos que esta ley actual es perfectamente mejorable pero en todo caso

no compartimos en absoluto lo que parece que pretende el gobierno de españa y en concreto

ciertamente todavía no ha llegado al congreso todavía no se ha planteado nada pero algunas cosas ya se han dicho y nosotros no estamos de acuerdo con esos planteamientos realizados

de ahí nuestra enmienda y puesto que no hay enmienda transaccional creo que es importante votar a favor de la iniciativa original del grupo socialista gracias eskerrik asko

gracias de nuevo señora presidenta yo al partido nacionalista vasco

a nadie he venido a exponer lo que el partido popular opina sobre esta reforma que ya le digo lo hemos dicho antes de que los españoles nos votaran y yo estoy de acuerdo con usted en todas las políticas de apoyo a la maternidad y que vayan dirigidas a proteger a las mujeres y a darles más libertad en su decisión

ese derecho al aborto porque efectivamente la señora díaz así lo reconoció el propio tribunal europeo de derechos humanos pone de manifiesto que ese derecho al aborto no existe mire señora urrea usted es la más joven de esta cámara pero utiliza el lenguaje más casposo de la misma el más casposo porque ese

de verdad creo que está absolutamente trasnochado

ustedes hablan de ingerencias no sé si es que en su grupo como tienen ingerencias externas como están teledirigidos piensan que el resto también lo estamos

no se ría no no se ría porque desde luego no ha sido cosa de risa

que hemos tenido privadas muchas mujeres las muertes de muchas mujeres por actos que ustedes todavía ha día de hoy siguen sin condenar así que para cinismo el suyo

llanos andreak dauka denok qué pasa que cuando no les gusta lo que les décimos su recurso es el insulto yo no les he insultado no he dicho

y señora sánchez no me ha contestado absolutamente a nada

de lo que le he dicho en la primera intervención a nada quizás porque a muchas de las cosas no tienen ustedes contestación usted habla de legislar

qué hacemos entonces como hay muchos otros delitos si hay muchos robos despenalizamos el robo sí sí usted lo ha dicho y sino revíselo y además lo ha dicho porque es lo que repiten ustedes como un mantra

lo sabía y claro no me ha hablado del tribunal constitucional en la segunda intervención

en los que establecía lo que yo le he dicho lo que yo le he dicho

y no nacido es un bien jurídico merecedor de protección

cuando hay una colisión deben ponderarse esos intereses y ver

por el otro y eso era la ley de supuestos y eso es lo que no existe esa ponderación de valores y de bienes jurídicos es lo que no existe

no existe de la misma manera que existe vida humana en esas primeras catorce semanas y ya le digo no lo décimos nosotros lo dicen

desde el punto de vista científico y usted habla de que nos saltamos

si yo no sé por qué ustedes modificaron la ley no sé a qué tipo de presiones o a qué tipo de intereses

felipe gonzález había estado un montón de años en el gobierno zapatero cuatro años

de un año antes a ver dicho la vicepresidenta que no existía una demanda social de modificar la ley del aborto un año más tarde la modifica y me habla de prioridades

de verdad usted me habla de que tenemos que atender a prioridades y me dice de hacer caso pero si ustedes no hicieron caso a nadie

y me dice usted de que los demás obviamos mire señora sánchez y no me quiero ir de esta cámara sin leer como nos gusta últimamente tanto las citas

no puede negarse la pertinencia a un juicio ético social y jurídico por considerarse que se trata de un asunto solo concerniente a la mujer hay que garantizar una libertad libremente querida pero también la protección del feto el estado tiene deberes éticos y jurídicos para con el feto por lo que debemos defender que es un bien jurídico constitucionalmente protegido que es el nasciturus la vida en gestación es una realidad distinta de la vida gestante que no es una parte del cuerpo de la mujer que no no es ni un órgano ni una extremidad

no estamos hablando de un algo estamos hablando de un alguien se trata de un ser humano en formación no puede haber un derecho al aborto y no sigo y sabe quién firma esto

lópez cans biólogo y maría josé pereda médica y magister en bioética

son cristianos socialistas del partido socialista a quien ustedes amenazaron y no pudieron hacer público este manifiesto

de retrógrados que todavía a día de hoy quieren volver a la ley de supuestos nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea euzko abertzaleak taldearen

fuimos valientes y dimos ese gran paso en el año dos mil diez hasta ese momento durante veintiocho largos años ya ningún gobierno señora llanos ni de un signo ni de otro
isiltasuna mesedez había movido un dedo para cambiar una ley que estaba permitiendo que se dieran situaciones de miles de abortos que se colaban por medio de un boquete lega

por tanto dejémonos de hipocresías haurdunaldiaren

si una persona tiene que pasar por ese trago que lo haga con unas mínimas condiciones dignas y de seguridad y por supuesto con la reforma que el actual gobierno plantea

se verá mermada en gran medida lo que se plantea es un paso atrás un retroceso